zubizarreta sartu da miren larrion ruiz de gauna

barrio baroja carmelo becerra carollo josé ramón

blanco de angulo eva bollain urbieta julen casanova alonso iker

damborenea basterrechea antonio de andrés guerra javier de bengoechea estrade juana egibar artola joseba

grajales rodríguez unai guanche suárez tinixara

larrion ruiz de gauna miren latxaga ugartemendia david

tellería orriols luis javier ubera aranzeta rebeka

urrutia oianguren aitor urruzuno urresti unai

en virtud de lo dispuesto en el artículo cuatro del reglamento del parlamento vasco y una vez que se ha acreditado ante la secretaría general del parlamento un número de parlamentarias y parlamentarios equivalente a un tercio de los miembros de la cámara

de septiembre de dos mil dieciséis a la sesión constitutiva del parlamento que se celebrará el próximo día veintiuno de octubre

del parlamento vasco y en la que se dará cumplimiento a lo establecido en los artículos cuatro y cinco en relación con el artículo treinta y siguientes del reglamento del parlamento vasco

artículo cuatro uno una vez haya acreditado su condición un número de parlamentarios y parlamentarias equivalente a un tercio de los miembros de la cámara

tres los parlamentarios y parlamentarias se reunirán en sesión presidida por la presidencia de la diputación permanente

cuatro uno de los secretarios o secretarias de la diputación permanente irá llamando a los parlamentarios y parlamentarias por orden de acreditación

a continuación la presidencia declarará abierta la sesión cinco al llamamiento anterior los parlamentarios y parlamentarias presentes exteriorizarán

en el presente reglamento así como del reconocimiento de los derechos que en el mismo se establecen

seis seguidamente uno de los secretarios o secretarias de la diputación permanente leerá el acuerdo de convocatoria del parlamento la lista de los parlamentarios y parlamentarias presentes

y los artículos del reglamento relativos al acto siete la presidencia de la diputación permanente llamará al parlamentario o parlamentaria de más edad

esta presidencia a su vez llamará de entre los y las presentes a los dos parlamentarios o parlamentarias que le sigan en edad y a los dos parlamentarios o parlamentarias más jóvenes para que en calidad de vicepresidentes y secretarios o secretarias

desempeñando todas aquellas funciones y atribuciones previstas para la mesa del parlamento cuando se planteen asuntos que no admitan aplazamiento ocho

nueve reanudada la sesión la presidencia de la mesa de edad proclamará los candidatos o candidatas con indicación de los parlamentarios y parlamentarias que los hubieran presentado diez seguidamente se procederá a la elección de la mesa de la cámara de acuerdo con el procedimiento previsto en este reglamento artículo cinco uno concluidas las votaciones los elegidos y elegidas ocuparán sus puestos

anunciará la convocatoria del próximo pleno y levantará la sesión dos

a la lehendakari o el lehendakari en funciones artículo treinta uno el pleno elegirá

dos se procederá en su caso a una nueva elección de los miembros de la mesa cuando las sentencias recaídas en los recursos contenciosos electorales supusieran cambio en la titularidad de más del diez por ciento de los escaños y así fuera solicitado por un grupo parlamentario tres

artículo treinta y uno uno la elección de la presidencia se verificará en primer lugar

un solo nombre en la papeleta de entre las candidatas o candidatos propuestos y resultará elegida o elegido quien obtenga la mayoría absoluta de los miembros de la cámara

se repetirá la votación entre las dos o los dos que hubieran obtenido mayor número de votos

las dos mayores votaciones todos ellos pasarán a la segunda votación salvo que renuncien expresamente a presentarse

tres en caso de producirse empate en la segunda votación se procederá a una tercera entre las candidatas o candidatos igualados en la que resultará elegida o elegido quien obtenga el mayor número de votos cuatro si en la tercera votación persistiera el empate

artículo treinta y dos uno una vez elegida la presidenta o presidente se procederá a la elección simultánea de las dos vicepresidentas o vicepresidentes

candidatas o candidatos propuestos y resultarán elegidas o elegidos por orden correlativo las dos o los dos que obtengan el mayor número de votos tres en caso de empate se procederá a una segunda votación entre las candidatas o candidatos igualados

de persistir nuevamente el empate se dirimirá en favor del candidato o candidata que formase parte de la lista más votada en las elecciones artículo treinta y tres uno una vez elegidas las vicepresidentas o vicepresidentes

se observará lo establecido en el artículo anterior para la elección de las vicepresidentas o vicepresidentes

elegida la mesa todos sus miembros serán proclamados por la presidencia de la mesa de edad y pasarán a ocupar sus respectivos puestos

egun on guztioi es un honor estar en la presidencia de la mesa de edad

este parlamento es inmensamente joven y por lo tanto la pasión y las ganas de trabajo se suponen invito a doña juana de bengoechea estrade por favor y

como miembros de esta cámara que me siguen en edad y a los compañeros julen

y lander martínez hierro que son los dos miembros más jóvenes presentes

y actuar hasta la elección de la mesa definitiva

conforme a lo dispuesto en el apartado ocho del artículo cuatro se suspende la sesión durante quince minutos para que los miembros de la cámara presenten candidaturas

una cuestión de forma y de fondo en virtud de lo contemplado expresamente en el artículo ciento ocho punto ocho de la ley orgánica

que proceda a la pregunta a los parlamentarios a través de la fórmula de juramento o promesa del acatamiento de la constitución española del ordenamiento jurídico que dimana y por tanto de nuestro ordenamiento jurídico muchas gracias señor presidente

y hablamos de esta propuesta